sí gracias señora consejera una pregunta previa sabe si

la guardia civil llevó una diligencia a tres colegios con los nombres y apellidos de todas las posibles víctimas tiene conocimiento de este hecho

usted insiste ha insistido inicialmente en que el profesor no está imputado efectivamente

sin estar imputado sin embargo ustedes hace unos días cuando este asunto sale a la palestra pública

deciden apartarlo por qué deciden apartarlo hace unos días y no cuando tuvieron conocimiento de estos hechos entendemos que se puso en riesgo a los niños y a las niñas el profesor

pero efectivamente ustedes tenían conocimiento de estos hechos y decidieron no apartarlo qué ha cambiado para que la semana pasada apartar a este profesor qué es lo que ha cambiado efectivamente reconoce que no existe un protocolo de actuación para estos casos

aplicado el protocolo por qué se mintió y en todo caso por qué no tenemos un protocolo de actuación para estos casos

ustedes han señalado que no tenían conocimiento de los casos de abusos cuando lo cierto es que tanto el ayuntamiento de vitoria como la propia fiscalía les informan a ustedes

es decir por qué mienten en relación a esta cuestión por qué dicen que no tuvieron conocimiento cuando el ayuntamiento de vitoria ya les había informado de estos casos

ni ha justificado la tardanza en realizar el cambio de centro de la niña y tanto que fue vigilado este profesor

en esta ikastola a la que se lleva a la niña en el mes de enero cómo puede decir usted que estuvo perfectamente vigilado y resulta que hacen coincidir

supuesto agresor y a la supuesta víctima esto merece una explicación cómo es posible que esto ocurra y por qué dijeron

cuando la ikastola ha desmentido estas afirmaciones de su departamento por qué dicen ustedes que se informó a la ikastola

ha dicho que efectivamente no fue informada por qué mienten es decir a parte de los errores que están perfectamente demostrados

por qué dicen cosas que no son ciertas por qué han tratado de engañar a la ciudadanía ya digo me baso en suyas y en la respuesta que se nos dio por escrito a una pregunta parlamentaria cómo es posible que al profesor se le aparte más de un año después de que ustedes tuvieran conocimiento de que habían existido o habían podido existir supuestos abusos es posible que se ponga en riesgo de esa manera a los niños y a las niñas cómo es posible que se permita que este profesor vaya de centro en centro

cómo es posible esto y todo esto ciertamente no ha sido aclarado por usted por eso vamos a registrar una moción para que este parlamento solicite al lehendakari la destitución de la consejera

clarísimos cometidos errores claros cometidos falta de diligencia actuaciones ciertamente lamentables

durante los últimos días por diferentes medios de comunicación no presentamos este tipo de iniciativas para

al gobierno e impedir que hechos semejantes puedan volver a producirse en el futuro eskerrik asko maneiro jauna uriarte andrea zurea da hitza

señor maneiro me parecen graves sus afirmaciones pero voy a intentar seguir dando respuesta a las cuestiones que ha ido planteando como le he dicho anteriormente

investigación que concluyó sin ningún indicio ni prueba de comportamiento incorrecto por su parte en consecuencia el caso se cerró tanto por el departamento como por la fiscalía sin embargo el departamento ha continuado haciendo un seguimiento cercano pero muy discreto de este profesor

por responsabilidad y de una manera discreta en atención a la presunción de inocencia del profesor y también para que si realmente hubiera algún delito

por lo que estaría en todo momento acompañado incluso por tres y cuatro personas en momentos puntuales

lo que otorgaba una mayor seguridad y garantía en consecuencia

sin necesidad de implicar de manera inmediata a la recién estrenada dirección del centro otorgándoles así el tiempo necesario para hacerse totalmente con las nuevas responsabilidades antes de informales de la situación señor maneiro es muy grave la acusación que está usted haciendo me acusa de mentir

nosotros trasladamos al parlamento la información de la que disponíamos en aquel momento

que es como se ha venido actuando en los anteriores cursos no obstante en este caso la inspección en base a su criterio profesional decide realizar directamente el seguimiento al detectar que se trata de una nueva dirección y que la situación está controlada

es si se podría haber evitado que coincidiesen nuevamente el profesor y la niña lo primero que tengo que decir es que lamento que esta situación se haya producido no es beneficiosa para nadie

en plenitud de sus derechos sin imputación alguna esta persona solicitó una plaza en vitoria gasteiz

o aquel otro como se ha llegado a insinuar la casualidad ha querido que se diera esta coincidencia la única manera en la que hubiéramos podido evitar esa circunstancia

es decir saltándonos nuestro propio sistema de adjudicación gainera

vista la alarma social generada entorno a este caso eskerrik asko eskerrik asko sailburu andrea

qué tipo de oferta pública de empleo va a realizar usted

valora positivamente la estabilidad de la plantilla de los profesionales de la educación este es sin duda uno de los factores favorables para la mejora del sistema educativo y en consecuencia para la mejora de la formación integral y de la educación de nuestros alumnos y alumnas

partiendo de ese convencimiento este departamento ha reclamado ante el ministerio

la competencia para adoptar las decisiones fundamentales en torno a las ofertas de empleo público y por supuesto que el número de plazas convocadas no esté restringido por la normativa estatal

en relación a las ofertas públicas de empleo dicha ley sigue manteniendo una limitación en cuanto al número de plazas que una administración educativa puede ofertar si bien la tasa de reposición actual se ha fijado en un cien por ciento de las bajas netas de empleados y empleadas docentes fijos que se produzcan en el año dos mil quince

ese porcentaje se queda corto para nuestros deseos años de limitaciones en este sentido han aumentado nuestras necesidades
desearíamos que el único límite fuera el que nosotros mismos nos pusiéramos como gobierno vasco y no el impuesto por el gobierno central eskerrik asko

sí egun on guztioi sí señora consejera yo estamos de acuerdo en su discurso teórico en relación a la

y su impacto sobre la calidad pero lo que ocurre es que su discurso su discurso es contradictorio con sus obras completamente contradictorio con su práctica el discurso y el recurso van por separado ha empezado el curso el curso escolar

prácticamente dos meses y usted todavía no se ha reunido con los representantes de los trabajadores sé que les ha convocado pregunta mediante para el cinco de noviembre

el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo que yo misma pude firmar con los representantes de los trabajadores vencido

usted no negocia nada con los representantes de los trabajadores y lo que ocurre con los representantes de los trabajadores es lo que ocurre con los trabajadores es decir el trabajador el docente

con buenos docentes con docentes estables identificables equipos docentes identificables usted hace calidad pero con docentes en los que hay más de un treinta por ciento de interinidad en este momento es decir en la anterior legislatura lo pudimos reconducir al diecisiete por ciento usted no ha hecho efectivamente ni oferta pública en el dos mil trece ni oferta pública en el dos mil catorce

seis mil interinos es más de un treinta por ciento de interinidad no es estabilidad en la plantilla docente eso no es calidad

no negocia con los representantes de los trabajadores usted tiene que hacer y tiene que atreverse a hacer una oferta pública de empleo de una cantidad equivalente a casi mil profesores mil la oferta una oferta de casi mil personas y además la tiene que anunciar cuanto antes

y no me diga lo del gobierno central porque con el gobierno central se negocia porque no habrá en este momento administración administración en toda la nación española que tenga más de un treinta por ciento de interinidad

por tanto solamente con jubilaciones y solamente con fallecimientos usted podría llegar según los cálculos que realizan los representantes sindicales

entonces yo lo que le hago es animarle con esta pregunta animarle a que se atreva

que lo anuncie pronto porque las personas tienen que tener derecho a preparar su examen para poder estabilizar

y vincularse a los planes de centro nada más muchas gracias

señora celaá como le he dicho en mi primera intervención compartimos plenamente la vital importancia de la estabilidad de los equipos docentes para una mejora continua de nuestro sistema educativo y la consiguiente necesidad de convocar nuevas convocatorias

a determinar el número de plazas preciso que será objeto de la convocatoria y el cuerpo o cuerpos docentes destinatarios de esas plazas y siempre con la mayor garantía jurídica y por supuesto hablando negociando como usted bien ha dicho ya tenemos previsto una reunión el día cinco en todo caso es necesario esperar al tramo final del año dos mil quince para conocer con exactitud algunos de los datos como los relativos a las jubilaciones y otras bajas no predecibles por diversas causas y poder definir el total de las plazas
puede estar segura de que ofertaremos el mayor número de plazas posibles le agradezco sus ánimos eskerrik asko

esan zuen enrique ramos donostiako udaleko hirigintzako zinegotziak da igual lo que diga la sade el ayuntamiento la diputación y el gobierno vasco

pero sí dará los pasos necesarios colaborará con las instituciones implicadas participando incluso en la cofinanciación de la misma si fuera necesario
y así se acordará para que esta se reconstruya de manera adecuada eskerrik asko uriarte andrea

en consecuencia el gobierno vasco ha comenzado a analizar la posibilidad de trasladar el barco a otro lugar no obstante el tamaño de la embarcación

hace que con toda probabilidad su coste sea superior incluso al coste total previsto en el informe de albaola para la intervención completa sobre el barco atxustegi

javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko

ruiz de arbulo jauna zurea da hitza gracias señora presidenta
señoras y señores consejeros señorías buenos días a todos señora beltrán de heredia hoy hace un año que se celebraban las elecciones de la ertzaintza hoy casualmente

de esas elecciones que recientemente una sentencia de lo contencioso administrativo de un juzgado de bilbao nos ha dicho que son nulas de pleno derecho

que las convocaban y que abrían el procedimiento electoral ni el procedimiento en sí

cuál es el criterio que va a tener el departamento a partir de ahora para dar cumplimiento a esa sentencia entendiendo que la sentencia que no ha sido recurrida por ustedes asumen el contenido de la misma

modificar la ley promover desde el gobierno la modificación de las normas que rigen los procedimientos electorales para que el procedimiento que usted convocó y promovió sea legal lo va a mantener igual o al revés someter

un nuevo procedimiento y cambiarlo para que no sean vulnerados de nuevo todos los derechos de los

sindicales y por supuesto cómo va a depurar las responsabilidades dentro del departamento por esa vulneración por esa nulidad
de todo este procedimiento o si es que asume usted directamente toda la responsabilidad al respecto gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko

septiembre del juzgado de lo social de bilbao recalca que las papeletas de votación de las elecciones sindicales deben llevar incluidos

sindicatos deben publicarse en el boletín oficial del país vasco y en este sentido concluye esa misma sentencia que las elecciones sindicales celebradas en octubre de dos mil catorce en la ertzaintza no pueden ser una excepción ahora bien es que fueron una excepción lo fueron en dos mil catorce y lo han venido siendo desde dos mil dos y en aquella ocasión del dos mil dos fue la junta electoral integrada por la administración por cierto por técnicos de la administración y por sindicatos los sindicatos mayoritarios de la ertzaintza donde se decidió por unanimidad que las papeletas ni incluyeran de los candidatos ni candidatas y que además se omitiera la publicación en el boletín oficial del país vasco

tablones de anuncios de cada una de las unidades bien es cierto y había un argumento sólido era una cuestión de preservar el anonimato era una cuestión

miembros de la ertzaintza y así se ha venido haciendo desde

con acuerdo de la junta electoral también en dos mil catorce pero esta sentencia ha declarado

el acuerdo de la junta electoral tanto ese acuerdo como las propias elecciones la sentencia dice como bien usted ha mencionado que no cabe interponer recurso contra la misma y por tanto el departamento no ha interpuesto ni va a interponer recurso son elecciones sindicales le quiero aclarar que el departamento en este caso se limita a facilitar la logística

haya un desarrollo normal de las mismas por tanto los verdaderos actores y los verdaderos interesados

desde el departamento ya hemos iniciado los contactos con los diferentes sindicatos para establecer una nueva fecha de elecciones eskerrik asko

gracias señora presidenta señora consejera no me ha respondido

en las mismas condiciones o van a promover un cambio legal para adaptarlas usted ha reconocido que las cosas se estaban haciendo mal en esa junta electoral hay técnicos de su departamento

no le han avisado de que hay que cumplir la ley e incluso en los procedimientos electorales incluso

dentro de la junta electoral que vulnera la ley habrá que cambiar la ley si es que se quiere seguir ese criterio pero no se puede continuar obviando lo que la legislación vigente y aplicable

eso nos lleva a que efectivamente las elecciones sean nulas no sé es que

para que adrede se hagan mal incumplan la legislación

eso es lo que usted me lleva a pensar y no me ha respondido tampoco va a depurar algún tipo de responsabilidad o usted asume directamente

esos comicios organizados desde su departamento estaban mal hechos y no va a exigir responsabilidad a nadie en el mismo muchas gracias eskerrik asko

la propia comisión electoral en este caso

junta electoral adoptó esa decisión por unanimidad en dos mil dos por unanimidad de todas las centrales sindicales incluso la que ha recurrido ahora incluso la que ha recurrido

es velar porque las elecciones se desarrollen con normalidad y efectivamente a la vista de esta sentencia que entendemos que no es recurrible porque así lo expresa en la propia sentencia

nuevamente los contactos para establecer nueva fecha de las elecciones lógicamente en cumplimiento de la sentencia y de las condiciones que establece la sentencia ahora bien tampoco quiero obviar que dos sindicatos han presentado

por tanto tendremos que estar también a expensas y a la espera de lo que manifieste el tribunal de las

javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

en este caso también los sindicatos vienen denunciando desde hace mucho tiempo una extraña manera una extraña forma de financiar a determinados agentes de la ertzaintza mediante un sistema de pago abono puesta a disposición de vehículos abono de kilometraje dietas etcétera

venimos oyendo en los medios de comunicación desde hace muchos años y después de tres años de gobierno me gustaría saber qué medidas de control interno ha puesto usted en marcha para evitar algo que antes solamente decían los sindicatos y que por lo visto ahora también la hacienda de control económico mediante un informe le

los mecanismos de control interno del departamento no están funcionando bien y que las cosas no se están llevado a cabo

no tener que hacer esta pregunta en pleno y que en un ejercicio de

una comparecencia en la comisión para explicar ese informe el escándalo que supone la prensa hablar esas palabras tan gruesas de

llevado a cabo durante años entre los mandos de la ertzaintza pero

señor ruiz de arbulo habla usted en la justificación

de casos de doble financiación y una vez más como usted ha puesto de manifiesto entramos en esa espiral perversa que se repite una y otra vez en este caso un sindicato también de nuevo

dicta sentencia en una entrevista de prensa y usted inmediatamente viene aquí y habla de casos de doble financiación a algunos

mire señor arbulo no se escude en denuncias ajenas si usted conoce si a usted le consta que hay casos de doble financiación denúncielos porque de lo que estamos hablando y lo que expliqué en mi comparecencia el diecisiete de junio de dos mil quince es de liquidación

y que tienen derecho a indemnizarse de acuerdo

lo que significa que estamos aplicando de una forma eficiente el decreto de indemnizaciones de dos mil doce

con los sindicatos es verdad con algunas imperfecciones tal y como señala la oficina de control económico es una auditoría administrativa y como tal la aplicamos para la mejora de nuestra gestión pero esto señor ruiz de arbulo no tendría que servirle para acusar a nadie de doble financiación y menos

permanente de algunos sindicatos una práctica que no tiene otra motivación que la

a los mandos del ertzaintza sin importar o quizás
la desacreditación de toda la institución eskerrik asko beltrán de heredia andrea ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

señora consejera nada más lejos de mi intención que desacreditar ni a un solo miembro de la ertzaintza ni a un agente de base ni a ningún mando intermedio

superiores ni a sus representantes sindicales como usted sí hace continuamente y ya vemos la buena

doble financiación es financiar mediante un sueldo recogido en los presupuestos y por el que se tributa a hacienda y mediante una gratificación diferente que en cualquier otro departamento de esta gobierno

o en cualquier empresa privada sí está sujeta a retenciones por ejemplo qué control interno

cientos de vehículos que están puestos a disposición veinticuatro horas al día

está sujeto a una regulación fiscal y tributa por eso hablo de doble financiación en este caso no se utilizan exclusivamente cual es el control que se hace para que se utilicen exclusivamente para desplazamientos oficiales usted sabe que no es así por qué no tributan por esa causa

y quienes no disponen de esos vehículos para su uso particular eso en cualquier administración o en cualquier empresa se tiene en cuenta

se notifica a hacienda yo no me imagino a los directores de los colegios públicos dependientes del gobierno vasco que tuvieran

para las autopistas que se les pague una visa o una tarjeta de crédito para el pago de la gasolina

a una emergencia dentro de su centro de trabajo pero en el cuerpo que usted dirige parece ser que eso sí que ocurre me gustaría saber cuáles son los controles que se hacen a parte de esas más de cincuenta mil liquidaciones de otros haberes diferentes

cientos repito de vehículos que disponen algunos agentes algunos mandos de la ertzaintza muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

insisto estamos hablando de gastos que adelantan

sean mandos o no y que debemos devolverles de acuerdo a un decreto de indemnizaciones donde están tasados

los conceptos de acuerdo a un decreto de indemnizaciones aprobado en dos mil doce y acordado o negociado con los sindicatos a raíz de los informes de auditoría de la oficina de control económico

medidas correctoras en aplicación de las dietas en el no pago de kilometrajes también hemos hecho cambios y adecuaciones para la correcta cotización y tributación de esos gastos de dietas gastos de desplazamiento gastos de via t como usted ha comentado aquí fíjese usted si hemos hecho cambios

las justificaciones insuficientes de gasto de hecho son menos bastante menos

sean incuestionables no tenga dudas y seguiremos modificando cuanto sea necesario el decreto de indemnizaciones para que se ajuste a las necesidades de servicio y al compromiso de trabajo que tienen todos y cada uno

pero es verdad es mucho más fácil sembrar dudas generalizar hablar de supuestas irregularidades de dobles financiaciones aunque no haya más clavo ardiendo que agarrarse a la compra de una camiseta de licra no sé el desvió de tres kilómetros respeto al google maps

las mejoras de gestión son evidentes y constatables

izaten ari direla para nosotros la preocupación y le hablo en nombre del gobierno

lo que ha pasado es muy triste e intentamos estar al lado de las personas y saber exactamente cual es la causa y la responsabilidad

hemos repetido en infinidad de ocasiones que este es un gobierno para las personas pertsona

que se han visto implicados en estos casos han actuado con celeridad y diligencia

consecuencias de una mayor envergadura tanto en el resto de pacientes de euskadi como en el resto del estado y probablemente de la unión europea estos profesionales

la evolución anómala de algunos de los pacientes podía estar causada no por un fármaco sino por un material sanitario el plerfluorooctano que se utiliza en intervenciones de reaplicación

y que es el único nexo común que hemos encontrado en todos los pacientes afectados en cuanto a las acciones concretas que se han llevado a cabo ante esta situación osakidetza como responsable de la atención sanitaria

ha desplegado desde el momento en que se sospecha la toxicidad del material utilizado

para evitar más pacientes afectados es necesario recalcar que la situación a la que se hace referencia no ha estado propiciada por una mala práctica médica o quirúrgica sino presuntamente por un defecto o una alteración probablemente en alguno de los lotes de un material quirúrgico que tampoco

ya que es de uso habitual en la cirugía vítrea y retiniana tanto en los hospitales públicos como en privados

como en otros servicios de salud tal y como me ha requerido y para que se entienda mejor

los hechos cronológicamente cronología que hicimos pública la semana pasada desde el departamento de salud

informativa y pese a que la responsabilidad de la investigación y de la retirada del producto no le corresponde al departamento de salud otras instituciones

observó una evolución anómala en algunos pacientes intervenidos quirúrgicamente durante la primera quincena

exhaustivo de los casos y de las posibles causas se advirtió que el nexo común en todos ellos podía ser la utilización del perfluorooctano de una determinada marca comercial en uno

concretos este comportamiento anómalo y las consecuencias sobrevenidas en ocho pacientes

llevaron a sus profesionales a trasladar inicialmente la sospecha a la dirección médica y desde ahí alertar a la unidad de farmacovigilancia

de manera paralela se toma la decisión cautelar

es decir a partir de la detección el material sospechoso dejó de utilizarse

trasladó de forma inmediata a la agencia española de medicamentos y productos sanitarios

las sospechas de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de vigilancia para los centros sanitarios con posterioridad la dirección de farmacia del departamento de salud recibió la alerta

agencia española de medicamentos y productos sanitarios emitida para el estado español y el resto de estados de la unión europea

definida como cese de la utilización de la comercialización y retirada del mercado del producto ala perfluorooctano fabricado por alamedics en alemania

elevado y fue inmediatamente difundida en los centros sanitarios implicados de euskadi

de alertas farmacéuticas de la dirección de farmacia del gobierno quiero recordar de nuevo que gracias a la diligente labor desempeñada por los y las profesionales del servicio de oftalmología

el producto es retirado cautelarmente del mercado la primera alarma hacía la agencia española de medicamentos y productos sanitarios

de nuestra agencia de farmacovigilancia a día de hoy podemos confirmar que en euskadi se han declarado trece casos de pacientes afectados ocho intervenidos en el hospital universitario donostia uno en el hospital universitario de cruces y cuatro más

de gipuzkoa todos ellos han sido intervenidos quirúrgicamente en el mismo periodo de tiempo y con el material denunciado aurreko

es un dispositivo de uso quirúrgico que una vez cumplida su función durante la cirugía se retira este material viene siendo utilizado en este tipo de intervenciones

en principio para estar en el mercado debe cumplir con todos los requisitos de seguridad vigilancia y control que se requieren para su comercialización y su posterior uso quirúrgico este es el principal motivo

es que el material implicado pueda pertenecer a uno o varios lotes concretos del producto

en todos los hospitales y la retirada del material sanitario estamos convencidos de que a fecha de hoy es muy poco probable

aparezcan nuevas personas afectadas no obstante y para esclarecer mejor los hechos

muestras del producto utilizado porque afortunadamente conservábamos para un análisis al instituto universitario de oftalmobiología aplicada de la universidad de valladolid un centro

para este tipo de materias es bastante significativo

no se ha registrado ningún otro caso relacionado con pacientes intervenidos somos conscientes vuelvo a insistir

que conlleva un perjuicio importante para las personas afectadas pero estamos convencidos que no es consecuencia de una mala actuación sanitaria

ni es consecuencia de un defecto de funcionamiento de los centros sanitarios me consta

están muy afectados y son también los primeros en lamentar el grave daño que han sufrido los pacientes

se han implicado al máximo por informarles y están realizando un seguimiento clínico muy estrecho tal como las circunstancias requieren desde aquí quiero reconocer la labor que han desempeñado los y las profesionales en el complicado

reitero se han evitado más casos le daré unos datos que ilustran con claridad el nivel de actividad del servicio de oftalmología en este caso del hospital universitario donostia

mayores centros en oftalmología en el conjunto del estado realiza anualmente más de noventa mil consultas lleva a cabo más

de las que más de cuatrocientos son cirugías de vitreo y retina

más complejas como la que nos ocupa concentra más del ochenta por ciento

de todo gipuzkoa es el centro de referencia para los hospitales comarcales del territorio cuenta con veinticinco

y personal de enfermería también sumamente cualificado creo que los datos ofrecidos son ilustrativos de la investigación realizada

de los centros de osakidetza vamos a estar como hasta la fecha al lado de los pacientes
los clínicos haciendo el seguimiento y dando la información clínica y los servicios públicos eskerrik asko darpón jauna denbora amaitu zaizu ubera

comparto muchas de las apreciaciones que ha vertido usted en el segundo turno por puntualizar yo no he transmitido que sea imposible

he transmitido que creo que lo que ha ocurrido como consecuencia del producto utilizado a partir de hoy creo que no vamos a tener más casos que los que hemos tenido no que esto en el futuro

los fármacos también tienen una distribución amplísima y probablemente

una estrategia de seguridad clínica para intentar minimizar los riesgos de efectos secundarios en la atención sanitaria porque imposible no hay nada

y que creo que habrán servido para evitar que se den nuevos casos como le he dicho a través de sus servicios jurídicos está dispensando una atención también personalizada a las personas afectadas que se han dirigido y estamos estudiando la mejor fórmula para dentro de la complejidad de responsabilidades entre quien garantiza la intervención y quien tiene la responsabilidad del producto y

es complejo porque estamos hablando de casi un tercio de los pacientes

han perdido la visión no están ciegos porque aquí estamos hablando de perder la visión de un ojo se han abierto procedimientos individuales de responsabilidad patrimonial se está manteniendo un contacto directo con quienes se han visto perjudicados y por supuesto se está atendiendo a la representación legal de aquellos pacientes que se han dirigido a osakidetza o han realizado ya una reclamación osakidetza banan banan

somos muy conscientes de la gravedad y probablemente de la irreversibilidad de las lesiones que han sufrido las personas intervenidas quirúrgicamente con

y en esas fechas y he expuesto detalladamente cómo han trascurrido los acontecimientos y también he lamentado y lo lamento en mi propio nombre y en el departamento de salud

por lo que entiendo que es positivo cualquier posicionamiento de acompañarles

y en particular los del hospital universitario donostia que con su preocupación y celo han dado la alarma

una evolución atípica en los pacientes celo que ha permitido que ha día de hoy

se retiren del uso evitando que otros y otras pacientes fueran tratados porque van a salir bastantes más pacientes probablemente del resto del estado y también en otros países de la unión europea

no hemos detectado más casos por lo cual aunque estamos pendientes de los análisis y la responsabilidad de la investigación y legalmente es así le corresponde al ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad y eso es lo que también va a determinar de una forma muy significativa como va ir la vía de la responsabilidades jurídicas pues entiendo consideramos altamente improbable que aparezcan más personas afectadas como ya le he dicho vamos a continuar desde los servicios jurídicos atendiendo de forma personalizada a todas las personas hemos abierto procedimientos de responsabilidad patrimonial

para cada uno de los casos y los hemos dejado en suspenso hasta tener el contraanálisis porque entendemos que eso beneficia en este caso al propio procedimiento de los pacientes

y de sus representantes legales la información que nosotros tengamos si se dirigen se la vamos a dar a los que se han tratado en el sistema público de salud

creo que habrá quedado clara y entiendo que se ha actuado con diligencia finalizo mi intervención agradeciéndole el tono de la intervención y reiterando a todas las personas afectadas nuestra solidaridad y nuestro apoyo besterik ez

osasun inbertsioei buruz otra vez una pregunta sobre inversiones sanitarias señor consejero el pasado dos de octubre le preguntábamos en relación a la inversión de ejecuciones

el informe de información presupuestaria de agosto en donde en una partida total de treinta y siete coma cinco millónes de euros se plasmaba que solo se había ejecutado seiscientos cincuenta y dos mil euros es decir apenas un dos por ciento

decía que a treinta de septiembre las obligaciones contabilizadas en inversiones

de estas partidas sin embargo señor consejero le tengo que decir que según el informe de situación presupuestaria de septiembre de dos mil quince la ejecución es de un millón seiscientos mil euros es decir un millón más

apenas un cinco por ciento por lo tanto señor consejero usted está faltando a la verdad una de dos o no nos está remitiendo a este parlamento

dando una información falsa en relación a los datos de ejecución presupuestaria que tienen que ver con todas estas partidas o no está diciendo la verdad en esta tribuna señor consejero nos va a decir

qué se esconde detrás de esta actitud señor consejero acaso tapar la inacción

de su gobierno del gobierno del partido nacionalista vasco en materia de inversiones eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

me vuelve a preguntar por lo criterios que llevan al gobierno a no proporcionar información veraz sobre la ejecución presupuestaria y se queda usted tan ancha

pero hágalo con criterio tómese el trabajo de hacer el análisis de la situación real

que se mandan no por el departamento de salud sino por el departamento de hacienda trabaje la documentación señora garrido lo que a usted le preocupa

sigue contando con la confianza de los vascos y las vascas en la difícil coyuntura por la que atravesamos una situación completamente distinta a la del gobierno

ni por inversiones ni por inmigrantes ni por copago farmacéutico

ni por la estrategia del ébola ni probablemente por nada

no se ajusta a la verdad en mi intervención

se lo voy a repetir para que lo apunte y lo consulte que las obligaciones contabilizadas

ascendían a treinta y tres coma siete millónes de euros es decir un setenta y uno por ciento del total asignado a día de hoy ascienden ya

no va a tener razón estos son los papeles que usted ha remitido al parlamento vasco estos son los papeles y aquí pone claramente el presupuesto de inversiones en diversos hospitales comarcas que es de treinta y siete millónes cuatrocientos sesenta y seis mil euros ejecutado

esto es lo que viene aquí en la información que usted ha remitido a este parlamento mes de agosto mes de septiembre no no pero me puede decir si esta información es cierta o no es cierta señor consejero está usted falseando estos datos o usted está engañándonos en esta tribuna no solo a este parlamento sino al conjunto de los ciudadanos vascos y aquí pone de los treinta y siete millónes seiscientos mil euros

por lo tanto usted señor consejero está faltando a la verdad de una forma clamorosa

al parlamento y a los ciudadanos vascos claramente o está engañando en esta tribuna o no está remitiendo una información certera desde luego

popular le instamos a que haga un ejercicio de transparencia y desde luego asuma la responsabilidad que ostenta sobre los datos de la ejecución presupuestaria

estos papeles señor consejero y dígame el grado de ejecución de estas partidas que yo le he vuelto a poner encima de la mesa esto evidencia una actitud ejercicio de escapismo una actitud de esconder la ineficacia de un gobierno de ejecutar sus propios compromisos qué credibilidad puede tener un gobierno que falta a la verdad de una forma tan evidente qué va a pasar con estas partidas señor consejero esos son los famosos recortes ajustes que nos están anunciando diversos

o el señor erkoreka cuál se va a ser la tónica de estos nuevos presupuestos desde luego

está automáticamente desincentivando el empleo y ya vemos claramente dónde están las prioridades de este gobierno y desde luego lo que constatamos es que los compromisos de este gobierno desde luego
no tienen nada que ver con la acción de gobierno que vemos día a día en la ejecución presupuestaria eskerrik asko garrido andrea

señora garrido aunque yo creo que en su grupo seguramente tendrá alguien que le pueda explicar los papeles mejor que yo

la ejecución del presupuesto de gastos contabilizado a fecha veintisiete de octubre las obligaciones reconocidas ascienden a la citada cantidad de treinta y cuatro coma uno millónes usted puede disponer de información en la que aparezcan partidas con crédito inicial cero en las que después

y otras partidas en las que sucederá lo contrario porque las partidas perdone que estoy hablando yo en la tribuna señora garrido correspondientes a las citadas inversiones tienen un carácter vinculante

permite que en unas partidas se pueda gastar más de lo inicialmente presupuestado o menos siempre dentro del límite total del presupuesto sabrá usted y sino apunte que las obras de tipo estructural son gestionadas desde la organización central de osakidetza mire usted

y esto se extiende también a los pagos el departamento ha contabilizado obligaciones por un importe

de los que más de treinta y dos son obligaciones reconocidas a favor de la dirección

de diferentes organizaciones de servicio creo que hemos disfrutado de su presencia en algunas de las inauguraciones de este año a las cuales no tengo la virtuosidad de hacerlo sin dinero y hemos abierto mire usted una resonancia

en la osi donostia las urgencias de la osi bidasoa el edificio de consultas externas de la osi goierri alto urola el centro de salud de zestoa los laboratorios de la osi barrualde galdácano tenemos obras iniciadas o pendientes de finalizar en biocruces en el centro de salud de miribilla en el carmelo

etcétera a usted le parece con esos papeles que le gusta agitar

adónde vas manzanas traigo erantzun didazu bai aipatu duzu

erraz eraso diezaiekeelako kobaneri por lo tanto

akp en ankara para que tome medidas inmediatas para que los suministros médicos esenciales los alimentos y la ropa puedan llegar a kobane

andanadas incesantes de las fuerzas de isis en los últimos meses kobane sigue en pie

sus habitantes siguen realizando una resistencia feroz y están decididos a defender su administración autónoma que es uno de los tres cantones de la administración autonómica

de carácter laico democrático no sectario y en pro de la igualdad de género la trágica verdad

parado en la orilla de bodrum conmocionó al mundo

desde hace un año por todo ello el parlamento se adhiere al world kobane day que se celebrará el próximo uno de noviembre

encarcelados únicamente por hacer política la primera es la política

encarcelada tras pronunciar un discurso el día de la marcha mundial de las mujeres

marcha a la que este parlamento también se adhirió también queremos denunciar la situación en la que se encuentra el preso político y el exalcalde de

el cual se encuentra preso por su militancia política y a favor de los derechos políticos y lingüísticos del pueblo kurdo en el caso de su situación es crítica debido a la enfermedad que padece y que no está siendo tratado en prisión